esta pandemia por otro lado desde el punto de vista social y sanitario es evidente que transcurridos más de quince meses desde la declaración de emergencia sanitaria

tras subidas y bajadas todo parece indicar sin que ello evite que puedan producirse

que se ha reducido la incertidumbre aunque haya que mantener la prudencia

y que la sociedad vasca afronta esta nueva situación con una renovada

gure artean jarraitzen duela la primera contribución de la nueva ley es reforzar la seguridad jurídica de las decisiones que deban adoptarse desde mañana mismo así

contará con la cobertura expresa de esta ley la segunda contribución de esta ley es preventiva los datos mejoran día a día ahora bien

si se produce un retroceso o una nueva variante provoca un incremento de contagios con esta ley estaremos mejor preparados la tercera contribución mirar al futuro en una situación equiparable que ojalá nunca

no empezaríamos de cero cuando hace cuatro décadas se aprobó el consejo asesor de protección civil de euskadi labi nadie pensaría que pudiéramos sufrir una pandemia

las instituciones y la sociedad contamos con una base sólida contrastada y consensuada para ofrecer respuestas más eficaces y con mayores garantías argi dago

gure gizartearentzat eraikitzailea eta eraginkorra den borondatea erakutsi du esta ley se suma a un contexto de mejoría

quinientos cuarenta y seis hoy es del entorno de ciento cinco

fue de ciento noventa y cinco hoy ayer fue de treinta y cinco en solo seis meses un millón doscientos mil personas han recibido ya una dosis de la vacuna

nos acercamos a la inmunidad de grupo este verano la conseguiremos

sin bajar la guardia manteniendo una prevención responsable manteniendo el espíritu abierto constructivo y de colaboración práctica que agradezco a elkarrekin podemos partido socialista

y partido popular ciudadanos que a pesar de sus posicionamientos han considerado necesaria una ley y esta ley hemos aprobado una ley

la prudencia nos va a ayudar en el presente y en el futuro eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

metáfora de un gobierno más centrado en parecer que toma decisiones que en tomar

y las cosas han cambiado cuando por fin han entendido que las propuestas de la oposición no eran descabelladas y creo que en este sentido en el de las vacunas hay que seguir hay que estar preparados ante las nuevas cepas y hay que volver a espabilarse

comparto señora iriarte también con usted la opinión directa expresada por la ciudadanía vasca

en dos mil veinte la satisfacción de la población vasca con su vida es de siete coma seis sobre diez a pesar de ser el año de la pandemia ha mejorado desde el siete coma uno del año dos mil catorce estudio sobre la gestión de la pandemia junio de dos mil veintiuno un setenta y siete por ciento de la ciudadanía vasca califica a osakidetza con un notable o sobresaliente

y solo el cinco por ciento le otorga un suspenso el noventa y seis por ciento de la ciudadanía aprueba la actuación de las y los profesionales sanitarios el ochenta y dos por ciento de la ciudadanía aprueba

este balance positivo de la sociedad vasca nos anima a seguir mejorando cada día eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza

lo hacemos a unas horas de que cambie su regulación vamos a pasar de una regulación a tiempo completo a una regulación a tiempo parcial

opción de llevarla ocasionalmente en función de lo que generen las circunstancias

una responsabilidad mayor a la ciudadanía porque tiene que optar

y por lo tanto dónde debe de protegerse y dónde debe de proteger

no significa que el instrumento deje de ser eficaz y que tenga además necesariamente que ser usado estamos viendo que hay países en el mundo que van más avanzados

de controles sanitarios y que sin embargo nuevos brotes nuevas cepas algunos abusos algunos malos usos están llevando a tener que dar algún paso hacia atrás y por lo tanto

y debe darle también el protagonismo la importancia que tiene a este instrumento que se ha mostrado como un eficaz regulador

como un eficaz regulador de esos elementos nocivos que están en el aire y que de ellos necesitamos protegernos

ha sido muy importante el papel de las administraciones públicas en este caso del gobierno vasco en este caso de la consejería que usted tiene

para que velando por la seguridad por las garantías por la eficacia de las mascarillas los ciudadanos y ciudadanas que han hecho un notable esfuerzo

social económico personal puedan tener garantías de que el instrumento es un instrumento adecuado y que funciona hace tres meses aproximadamente tres meses menos un día algo así

se anunció en qué líneas se iba a hacer una campaña de control y de garantías sobre la calidad de las mascarillas tres meses después eso está hecho y es necesario conocer esos resultados porque

por el camino del fraude por el camino de la irregularidad en relación con este producto tan imprescindible para

y por lo tanto es importante que como homenaje también a los propios ciudadanos que durante mucho tiempo tenido que llevar este instrumento y que tendrán que seguir llevando qué mejor homenaje a ese esfuerzo que garantizarles desde las administraciones públicas

está a la venta la que se puede adquirir en los distintos establecimientos sí cumple con las normas con las garantías y que por lo tanto es eficaz

pregunta señor hurtado y yo creo que en un ejercicio de transparencia hacia la ciudadanía es importantísimo conocer cuál ha sido
el resultado de esta campaña muchas gracias eskerrik asko prieto jauna erantzuteko

egun on guztioi y gracias señor prieto por dar la oportunidad de explicar hoy aquí la situación de la campaña sancionadora que efectivamente tuve la oportunidad de anunciar en esta misma cámara a finales de marzo

y hacerlo efectivamente justo hoy cuando se ha publicado el real decreto ley trece barra dos mil veintiuno por el que se modifica la ley dos barra dos mil veintiuno de medidas urgentes de prevención de contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid hemeretzi

gracias a un proceso de vacunación un proceso de vacunación que está siendo un éxito gracias al trabajo colectivo de ciencia de profesionales y de instituciones ayer conocimos el nuevo record de setecientos treinta y tres mil doscientos cuarenta y cinco dosis puestas en toda españa

labi o las que hemos conocido hoy no nos pueden hacer bajar la guardia porque el virus sigue todavía con nosotros

y por tanto la mascarilla también nos va a tener que acompañar durante bastante tiempo las mascarillas dejarán de ser obligatorias en exteriores donde puedan mantenerse la distancia pero siguen siendo una herramienta fundamental

es importante recordar su papel necesario en la pandemia han evitado miles y miles de contagios y lo van a seguir haciendo porque van a seguir siendo necesarias

y ante esta situación las autoridades competentes en control de inspección de mercado debemos estar especialmente vigilantes y así lo estamos haciendo

momento desde el punto de vista de medidas sanitarias también de evolución de mercado y del propio producto

y detectamos muchos incumplimientos en el etiquetado y por ello anunciamos que comenzaríamos una nueva campaña con carácter sancionador

desde euskadi hemos querido abordar esta campaña con rigor y por ello ha sido la más amplia realizada por las comunidades autónomas

dada la polémica sobre su eficacia y la extensión de su uso y segundo porque hemos querido incluir un amplio de muestras para su envío al laboratorio además del control de etiquetado por tanto esta campaña de inspección de mascarillas higiénicas ha analizado dos parámetros y la filtración bacteriana los inspectores han visitado establecimientos físicos en los tres territorios y se ha realizado la toma de muestras de veintiocho modelos diferentes de los cuales ocho eran de rejilla pues bien la conclusión de la inspección es que

incumplen la normativa de filtración bacteriana de la filtración

ninguno de los ocho modelos presentaban una filtración superior al veintisiete coma cinco y algunos

ante un incumplimiento de estas características desde kontsumobide hemos procedido a inmovilizar esos modelos de mascarilla de rejilla y retirarlas del mercado en euskadi además

para informar y advertir al resto de comunidades autónomas por otro lado en el resto de mascarillas higiénicas tanto reutilizables como de un solo uso de los veinte modelos analizados tres incumplían la filtración bacteriana con porcentajes que van desde el setenta y seis al noventa y uno cuando deberían ser del noventa en las de un solo uso

en el resto de modelos han pasado correctamente la prueba de laboratorio

algunos incumplimientos de etiquetado que son subsanables en estos momentos la campaña se encuentra en una fase de alegaciones por parte de las empresas y de cumplimiento de los plazos

y queremos asegurarnos de que en todo momento se respeten los derechos de las personas consumidoras con las garantías legales y los procesos lleguen a buen puerto nos encontramos ante una situación extraordinaria en que las autoridades sanitarias y las autoridades de consumo debemos seguir extremando el

egun on guztioi sailburu andrea durante los próximos meses de verano

algunos servicios y horarios de atención a la ciudadanía en la sanidad pública es una política que nosotros vamos a llamar de recortes estivales que el gobierno vasco lleva a cabo todos los años cuando llega el verano una política que perjudica a derechos básicos de atención sanitaria de la ciudadanía

y recortes de algunos servicios que se deben en nuestra opinión a que el modelo del gobierno vasco

frente a determinadas necesidades sanitarias este año

cobran en nuestra opinión una especial importancia son particularmente graves porque suponen un mayor impacto en una situación donde tanto la salud como la atención sanitaria están viéndose duramente afectadas por los largos meses de pandemia meses de retraso en la atención sanitaria a las personas y una sanidad pública que sigue estando permítame la expresión en estado de alarma de alguna manera cómo se va a recuperar

perdido en la sanidad a causa de la pandemia si seguimos aplicando este tipo de recortes en verano como si no hubiera pasado nada le preguntamos si piensa mantener el gobierno vasco esa política de recortes estivales en la sanidad pública este verano a pesar de la necesidad de mayor atención sanitaria provocada por la pandemia

legebiltzarreko presidente andrea legebiltzarkideok lehendakari egun on no es cierto que se vayan

el cuidado de la salud de la ciudadanía sigue garantizado ahora bien

a la realidad de la demanda no sería razonable mantener la misma intensidad en la prestación de servicios por ejemplo en consultas de atención primaria se reduce en al menos un treinta y tres por ciento durante el periodo estival en estos momentos la demanda de la pandemia en el ámbito hospitalario se ha visto mejorada seguimos en un escenario dos pero no sigue siendo la misma intensidad el esfuerzo en la atención primaria ha sido ingente en tiempo pero en estos momentos la incidencia también ha bajado donde sí

es en la vacunación y ahí estamos poniendo todos los medios no se reduce el servicio porque no se reduce la demanda a lo sumo reordenaremos los puntos de vacunación para ser más eficientes ante la previsión

administrar al mismo tiempo que se nos suministra eskerrik asko

no puede ser de ninguna manera un argumento para los recortes

y entre otras cosas porque estas últimas semanas han estado vacunando

y no estaban en marcha todavía esos recortes estivales nosotros pensamos que acortar el tiempo de apertura por ejemplo de los centros de salud

en sestao en la osi bilbao basurto pero que pensamos que se va a hacer de manera generalizada a nosotros nos parece un recorte y es un recorte que afecta a los servicios de la ciudadanía nosotros vamos a insistir también en una idea

hay que tener cuidado con la demanda a nosotros esa gestión estadística y más en estos momentos nos parece peligrosa sabemos que durante la pandemia con necesidad de acudir a la sanidad pública no lo ha hecho por diferentes razones entre otras por la situación excepcional en la que se encuentra

a la sanidad pública nosotros pensamos que esto es un recorte en los derechos de la población que dejan de tener un recurso sanitario tan importante como es la referencia de su centro de atención primaria y por otra parte al tener

en dichos centros de urgencias y a la vez se disminuye la calidad asistencial de la población al contar con menos recursos sanitarios

a la falta de personal pero nosotros pensamos que la solución a la falta de personal no puede buscarse en el recorte en nuestros ambulatorios y centros de salud en el verano y desde luego tampoco en la precarización de las condiciones laborales porque esto afecta a las condiciones laborales de las y los trabajadores de osakidetza

negociar este tipo de medidas lo están denunciando ellas y ellos estos días nosotros les pedimos que no cometan ustedes este error en este momento necesitamos más sanidad pública no menos sanidad pública independientemente de la época

pero este año como le decía sobre un sistema de salud duramente afectado por la pandemia es decir necesitamos este verano más sanidad pública para recuperar el tiempo perdido no menos que es lo que parece que están haciendo ustedes porque las personas
no eligen cuando ponerse enfermas y en verano lógicamente también lo hacen eskerrik asko hernández jauna

estival suele reducirse es un hecho y de hecho antes se lo mencionaba consultas hacendadas en medicina suelen disminuir en al menos un treinta y tres por ciento con lo que venimos atendiendo en invierno y eso ocurre todos los años y este año también ocurrirá

queremos que el personal descanse yo también queremos que el servicio se mantenga yo también

cuadrar la ecuación contrate a personal de sustitución y no es una excusa el decirle que no hay tanto como nos gustaría es una realidad pero también es una realidad que nuestra obligación es ajustar a la demanda

por eso para poder encajar sus deseos con los míos con la realidad del servicio y con el personal disponible se adecúan los horarios

ocurre que no es el mismo el ritmo de demandas según la temporada del año no siempre para eso

ha sido igual siempre el nivel de asistencia el cuidado de la salud está garantizado para toda la ciudadanía con carácter general lo que se hace en los centros de salud

los centros con horario habitual de ocho a veinte horas en verano están abiertos de ocho a diecisiete y los centros con el horario habitual de ocho a diecisiete horas en verano están abiertos de ocho

la atención se reduce en unas horas ajustando a esa demanda

y por ello contrataremos allí donde sea necesario siempre que exista personal disponible

la vacunación sigue requiriendo de contrataciones extraordinarias porque tiene una demanda extraordinaria y nosotros con todas

mantenemos lo más rápido posible ese servicio porque es

parece que ha reanimado el llamado nuevo estatus como serpiente de verano no está mal pero lo que nosotros queremos saber es si el pretendido nuevo estatus contará con el beneplácito de todo el gobierno vasco y en particular el suyo lehendakari hace dos semanas decidió usted no contestar porque el tema no estaba de forma

hoy espero que conteste de modo explícito a una pregunta explícita al caso desde bildu ya le han recordado con quienes pueden adentrarse en esos terrenos pantanosos con ellos y con nadie más en cataluña ya hemos visto hasta dónde puede llegar el dislate y los efectos de tales que tiene sobre la sociedad

lo que pasa cuando los nacionalistas más irresponsables se ponen a reventar el país ignorando su realidad plural

cómo valora el impacto que pueda tener sobre la estabilidad y convivencia la reactivación del debate en torno a un pretendido nuevo estatus político para el país vasco

la idea de reactivar este debate político aquí y ahora aquí en este parlamento donde reside nuestra soberanía ahora en un momento de transformación global

la imposición o la negación del diálogo sí provocan problemas la normalización del debate y la negociación política es una profundización de la democracia

quiere el debate por supuesto sobre este estatuto pero queremos saber qué tipo de estatuto qué tipo de debate quiere usted señor ayer mismo el señor ortuzar elevaba la voz tratando de coger la ola catalana

toda la atención de su gobierno con mayor o menor acierto durante un año pero en cuanto las cifras han dado un respiro voces autorizadas

y no hemos sido nosotros lo que no vamos a hacer es mirar para otro lado y las cartas han quedado repartidas muy pronto su socio de gobierno socialista dice que no quiere saber nada del tema si ese estatuto va por determinados derroteros

de ese modelo que llegaron a encajar en la pasada legislatura queremos saber si usted mirará para otro lado y dejará discurrir el debate de la mano de bildu en busca de la ruptura o si defenderá como lo hacemos en mi grupo el partido popular y ciudadanos la convivencia el entendimiento entre vascos

han hecho posibles durante todo este tiempo entiéndame bien lehendakari aquí no somos nuevos

como el plan de ibarretxe o las ensoñaciones melancólicas del nacionalismo más trasnochado nada nos pilla de sobresalto pues

a la sociedad usted lo sabe menos independentista y menos amiga de aventuras inútiles en varias décadas y por si faltaba algo el espejo catalán ha dejado claro lo que una sociedad próspera democrática y plural puede esperar de una deriva como esa

o se defienden marcos donde quepamos todos los vascos todos o se opta por escenarios de ruptura que siempre será ruptura entre vascos mucho antes que ruptura de los vascos con el resto de los españoles mucho antes

y con cuánta responsabilidad actuará la mayoría de los vascos queremos que esté con la convivencia usted con el entendimiento con la estabilidad y la prosperidad de la sociedad vasca y no con la ruptura y no con el enfrentamiento entre vascos que preconizan los irresponsables de siempre

que nos ahorre a los vascos recorrer de nuevo todos esos caminos a ninguna parte

de sus socios de los demás grupos aquí presentes y ahora queremos saber la suya como lehendakari

hasta ahora su posición es como algunos dicen como el del depende no yo le digo que entre convivencia y ruptura el depende es irresponsabilidad lehendakari por eso le pido que en su segunda intervención no eche balones fuera y aporte irresponsabilidad

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz permítame que le diga que a mi juicio usted sigue anclado en el pasado tantas referencias a lo anterior y en todo caso le recuerdo que hemos consumido dos décadas del siglo veintiuno

e incesantes globalización crisis económica pandemia transiciones tecnológica y digital energética y ecológica reto demográfico agenda dos mil treinta

cualquier país debe plantearse las herramientas con que cuenta para adaptarse a un mundo cambiante y en proceso de transformación o siguen ustedes defendiendo que el estatuto ya está cumplido señor iturgaiz o siguen ustedes defendiendo que no nos corresponden más transferencias

además de cumplido nuestro autogobierno debe ser actualizado actualizado

el pueblo vasco no renuncia a los derechos que le puedan corresponder en virtud de su historia que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico

más y mejor autogobierno es sinónimo de estabilidad y convivencia contribuirá a seguir mejorando el bienestar y las condiciones de vida de nuestra sociedad para eso ha de servir el debate sobre la actualización de nuestro autogobierno lamentaría que se quedaran fuera de este proceso anclados en el pasado mi invitación es que atienda

quien afirma literalmente defiendo un ideario y unos principios y si eh bildu o vox

podemos coincidir fin de la cita esta es la esencia de la política defender un ideario

señora presidenta lehendakari consejeros señorías buenos días a todos

hoy vengo a hablar de pandemia de su gestión de la pandemia del coste que está teniendo para amplios sectores de nuestra economía

para acoger en bilbao encuentros de la selección española sus desorbitadas exigencias hicieron imposible que la eurocopa desembarcara en la capital vizcaína con los hinchas la actividad

y ahora perdida ya la contienda europea y el dinero se saca de su chistera la rebaja de restricciones para el acceso de público a competiciones deportivas

más afectados por su empeño en que bilbao no acogiera partidos de la selección española eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna erantzuteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez ese es el quid la cuestión acoger a partidos de la selección española

sede para otras tres selecciones de fútbol en todo caso señora martínez le agradezco que sepa de mis gustos

pero también le diré que las medidas adoptadas por las instituciones vascas han sido las adecuadas en todo momento primero el año dos mil catorce cuando se presentó y defendió la candidatura de bilbao a la eurocopa

se establecieron los requisitos sanitarios para preservar la prioridad de la salud pública y tercero cuando se ha defendido la posición de las instituciones vascas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

señor lehendakari hay dos palabras que defienden su gestión de la pandemia improvisación y arbitrariedad

puso como excusa que no se cumplían sus exigencias para que en las gradas de san mamés hubiera público recuerdo que era un treinta por ciento lo que pedían sus exigencias en aquel entonces eran que la incidencia del coronavirus en el país vasco rondara los cuarenta positivos por cien mil habitantes

que la ocupación de camas uci estuviera por debajo del dos por ciento y que la trazabilidad de casos fuera superior al noventa por ciento la uefa por supuesto consideró abusiva sus condiciones y se llevó a sevilla el negocio y el escaparate que podía haber sido bilbao usted sabía o debería haber sabido que la uefa no admitiría sus exigencias

perder un impacto directo de al menos sesenta y uno millónes de euros en hoteles restaurantes transporte comercios y servicios turísticos de todo tipo inyección económica que sí han recibido esos sectores en sevilla

pérdida de un escaparate en europa y en el resto del mundo en un momento de especial necesidad

dejar pasar una oportunidad de oro para la reactivación de los sectores que con mayor dureza han recibido el fatal impacto de las restricciones que usted ha ido decidiendo

usted señor urkullu es el primer el principal responsable de este tremendo agujero que no puede compensar por supuesto la indemnización por trabajos realizados

la excusa ya la conocemos la realidad de la pandemia era otra había que tomar decisiones difíciles

pero la realidad es que ahora frustrado el negocio sí ve con buenos ojos el público en los estadios y el impacto de la pandemia es superior al que dibujaban sus condiciones imposibles exigía una incidencia de menos de cincuenta y hoy estamos por encima de esta cifra exigía que estuviera vacunado el sesenta por ciento de la población y apenas alcanzamos el cincuenta por ciento

exigía una trazabilidad del noventa y no llegamos al cincuenta todo ello le confirma usted como el principal responsable de tal despropósito

responsable de que bares restaurantes hoteles museos taxistas no puedan beneficiarse del balón de oxígeno que está siendo la eurocopa

si estaba mal asesorado señor urkullu prescinda de sus asesores

es por su culpa termine usted la frase muchas gracias eskerrik asko martínez andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez le ha faltado terminar a usted su frase responsable de que la selección española no juegue en bilbao eso le ha faltado

mire primero las mismas instituciones y las mismas personas que defendimos la candidatura de bilbao en dos mil catorce hemos defendido los requisitos para acoger los partidos y hemos avalado el acuerdo alcanzado con la uefa acuerdo alcanzado con la uefa no hemos cambiado

hoy padecemos una pandemia que condiciona toda nuestra vida comenzando por la salud pública segundo los requisitos establecidos para acoger los partidos de la eurocopa en bilbao

el día dieciocho de abril en aquel momento la tasa de incidencia era superior a los quinientos casos por cien mil habitantes cinco veces superior a la actual

al criterio científico y técnico de las personas profesionales expertas siempre

que la selección española debería haber jugado en bilbao qué pretende usted sugiere que las instituciones deberíamos de haber rebajado las recomendaciones de las autoridades sanitarias

sería bueno que se fijara en los datos de la dirección de salud pública del ministerio de sanidad de los datos actuales por comunidades autónomas y comparara también en referencia a lo que usted plantea en esta pregunta

y las instituciones vascas promotoras este acuerdo es beneficioso en todos los sentidos primero

todos los gastos ocasionados por la presentación y preparación de la candidatura segundo la uefa se compromete a celebrar sí dos finales europeas en bilbao

y de la champions femenina en veinticuatro y veinticinco estas dos finales se celebrarán en san mamés

espectadores podemos estimar por lo tanto que podrían acudir más de cien mil personas compare usted el retorno potencial

con el de las treinta y seis mil personas que han podido acudir a los tres partidos celebrados en sevilla

a lo largo de todos estos años desde el año dos mil catorce incluidos este último año y medio de la pandemia y el acuerdo alcanzado es el mejor aval recibido el balance final del acuerdo alcanzado por lo tanto es positivo

centrar en que el retorno resulte lo más beneficioso posible también desde el punto de vista económico con este objetivo vamos a seguir trabajando juntos las instituciones vascas

todas las instituciones vascas para que euskadi sea un referente para eventos también deportivos internacionales y podamos ser una de las sedes del mundial de fútbol de dos mil treinta

mendia le formulamos la misma pregunta que hoy nos vemos en la necesidad de volverle

de lanbide a la conocida reforma de lanbide que parece ser que nunca llega sabemos de la intención de este gobierno y en concreto de su departamento como decía de la intención de proceder a realizar una reforma integral de lanbide no ahora sino ya la pasada legislatura tenemos el diagnóstico de la situación y es preocupante hay que señalar que ya era preocupante en la legislatura

reconoció en la contestación que ya me dio el pasado mes de noviembre nos hablaba de transformar de cambiar lanbide para que fuera eficiente en la formación orientación activación para el empleo y en la gestión y tramitación de las prestaciones nos decía entonces que tenía un mapa ya completo

por eso señora consejera falta de una vez por todas materializar esos

ponerle fecha pasar a la acción por eso le volvemos a preguntar qué criterio va a seguir su departamento para transformar lanbide en un servicio eficaz a la hora de gestionar las prestaciones económicas previstas en la ley para la garantía de ingresos y la inclusión social

en un servicio eficaz también en la activación para el empleo eskerrik asko garrido andrea erantzuteko mendia andrea zurea da hitza

señora garrido ya siento que no tenga noticias nuevas sobre la transformación de lanbide y como usted misma reconoce hace siete meses exactamente me formuló exactamente la misma pregunta solo que en ella la única novedad que incorpora en la pregunta de hoy es que no tiene noticias de cambios en lanbide el resto es idéntico

he tenido reuniones privadas con usted igual que con el resto de los grupos de esta cámara y además de la primera comparecencia donde expliqué las líneas estratégicas del departamento y además de la comparecencia de presupuestos

para explicarle lanbide hobetzen el programa de mejora de lanbide le he ofrecido recientemente también la posibilidad de tener una reunión

y también como sabe usted porque estuvo presente en ese debate tuvimos ocasión de debatir

dos mil treinta con lo cual también hubo oportunidad de hacer aportaciones por parte de todos los grupos de esta cámara para enriquecer una estrategia que mira al año dos mil treinta por lo tanto señora garrido la transformación de lanbide está formada por muchas piezas

enumerando y comunicarle que estamos dando muchos pasos

el eje central de las políticas activas de empleo en euskadi y que además lo hemos hecho de la mano de los agentes sociales y económicos eskerrik asko

sí señora mendia pero lo que usted me está diciendo ahora claro que me lo ha dicho me lo ha dicho en privado lo ha dicho en público y no solo he tenido ocasión de escucharlo

en este parlamento pero es que me da la sensación de que no avanzamos mire la pasada legislatura la consejera que le precedió en el

al inicio de la legislatura que los dos principales objetivos del departamento eran la reforma de lanbide

ambos compromisos no se cumplieron la pasada legislatura yo desde luego confiaba en que con el cambio hubiera un cierto empuje a estas

pero es que seguimos sin avanzar mire en la estrategia vasca de empleo dos mil treinta ya se habla del diagnóstico y se señala del escaso desarrollo de la cartera de servicios a las empresas dentro de lanbide se habla también de que el servicio vasco de empleo está muy volcado en la gestión de la rgi y un poco estreñido por la rigidez administrativa en la que se ve obligado a actuar

y a la relación y servicios con las empresas

se habla de múltiples cuestiones en las que se señala que lanbide no está funcionado adecuadamente y no está cumpliendo los objetivos encomendados se habla de la mejora y transformación de lanbide como instrumento público nuclear del sistema vasco de empleo es decir el dieciséis de abril del dos mil veintiuno el mismo diagnóstico que en noviembre

en las resoluciones aprobadas a propósito del debate de la estrategia vasca de empleo en comisión también se habla de una profunda remodelación de lanbide yo lo que le pido hoy señora consejera

el cumplimiento de estos objetivos cuándo ya se va a pasar a la acción el diagnóstico lo tenemos pero falta ya ponerse manos a la hora

le quiero decir que cuando en noviembre le formulé esta pregunta eskerrik asko garrido andrea erantzuteko mendia andrea zurea da hitza

un puntito catastrofista es legítimo es una opción pero realmente no es la realidad que estamos viviendo en euskadi las cosas van razonablemente bien la vacunación va bien los datos del desempleo van bien y la transformación de lanbide va y este gobierno tiene

clara y sobre todo tiene estabilidad y confianza para llevar adelante esa hoja de ruta y le decía que la transformación de lanbide va yo la conozco desde hace muchos años en esta cámara por lo tanto no le voy a dar

relacionadas con la mejora de lanbide con la mejora de los servicios

en enero acordamos en el consejo de administración de lanbide el proyecto lanbide hobetzen la mesa de diálogo social ese mismo mes aprobó un programa nuevo

de trabajadores de sectores en crisis que es una nueva forma de trabajar en lanbide en febrero me reuní con usted y con el resto de grupos para explicarles lanbide hobetzen

para crear una dirección de prestaciones e inclusión que eso sí es un cambio directo en lanbide y también crear la unidad de coordinación e información en lanbide

aprobamos la estrategia vasca de empleo que como usted conoce y bien ha señalado ha sido debatida en esta cámara en el mes de mayo en el mes de mayo pusimos el anteproyecto

como le he ofrecido cuando quiera se lo explicó en junio hemos convocado el foro de empleo y hemos dado ya los primeros pasos para iniciar la elaboración de la ley del sistema vasco de empleo que también está íntimamente ligado a la mejora de lanbide y de las políticas activas de empleo en este país

estamos volcados en la reorganización interna de lanbide para un mejor funcionamiento estamos volcados en su estructura en la mejora de las oficinas

lanbide y también pongo en su conocimiento aunque ya lo he dicho en numerosas ocasiones en esta cámara

enplegu publikoaren egoera kaskarra dela por lo tanto y para hablar de las escandalosas tasas de temporalidad en la administración pública vasca no es necesario dar muchos datos la importante dimensión del problema es de sobra conocida

casi la mitad de la plantilla trabajan para la administración pública en situación de temporalidad y en la mayoría de los casos en situación de abuso o fraude esto quiere decir que la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras mediante contratación temporal están cubriendo trabajos estructurales y permanentes en la administración pública

mientras hace pocas semanas la señora consejera de empleo idoia mendia presentaba la estrategia vasca de empleo dos mil treinta con el empleo de calidad como eje central resulta que la administración pública lejos de ser un ejemplo en el respeto a la estabilidad en el empleo se ha convertido en la empleadora con las tasas de

esto es la administración hoy es el ejemplo de lo que en materia de empleo no debe de hacerse y esto está ocurriendo en la administración general en la administración educativa

en lanbide en osalan servicios públicos básicos y esenciales se están prestando

de inestabilidad de la plantilla y hace incluso muchos años en muchos casos hace seis meses en otra interpelación sobre esta cuestión preguntamos por las intenciones de su consejería y del gobierno vasco

afectadas viven en la incertidumbre y llevan demasiado tiempo esperando interpelazio hartan sailburu andrea galdetu genizun

para poder afrontar la aprobación y la realización de un proceso de consolidación y que precisamente por ello se había remitido con la mayor agilidad posible a la cámara

disposiciones adicionales relativas a la consolidación del empleo temporal en las administraciones públicas vascas nos dijo también que todos los grupos

y que consideraban que el proyecto tenía el aval jurídico suficiente para su adecuada tramitación pues bien hasta la fecha de hoy nada de esto que nos dijo hace seis meses se ha cumplido nada aitortu beharra dago

por lo tanto señora garcia el problema no es que no haya propuestas sobre la mesa para reducir la temporalidad gustosamente voy a explicarle cuáles son las medidas sobre las que estamos trabajando

ya las hemos planteado en el ámbito de las mesas de negociación colectiva como primer paso quiero poner de relieve la necesidad de convocar de manera urgente y excepcional

donde se tenga en consideración de manera específica la experiencia desarrollada en nuestra administración convocante respetando en todo momento el marco normativo vigente

en este proceso se reconocerá en la medida de lo posible la experiencia de las personas que llevan tiempo trabajando en nuestra administración

un colectivo que como siempre he señalado aporta una experiencia y un conocimiento fundamentales para el mejor desarrollo de la actividad del servicio público este gobierno

impulsando la inmediata tramitación del proyecto de ley de cuerpos y escalas en el cual se recogen las herramientas e instrumentos dirigidos a avanzar en la consolidación del empleo público

creo oportuno poner en valor que hemos aportado medidas concretas recogidas en un proyecto de ley

no se nos puede achacar que no hayamos sido proactivos a la hora de plantear propuestas propuestas concretas y serias

este proyecto de ley de cuerpos y escalas está ahora mismo en tramitación parlamentaria

para animarles a llegar al más amplio consenso posible más allá del ámbito sindical y el parlamentario

me refiero a las relaciones con el estado en cuanto a los posibles cambios y desarrollos normativos en torno a esta cuestión de la interinidad sin ir más lejos ayer mismo

de primera mano y en el contexto de la conferencia sectorial de administraciones públicas que se dé cobertura legal

nuestros procesos de consolidación esto podría ser posible con total seguridad jurídica a través de una modificación del estatuto básico del empleado público de esta forma se reduciría la temporalidad y podrían reconocerse específicamente los servicios prestados por el personal interino y laboral temporal en las administraciones públicas y es que a esta situación se ha llegado como consecuencia en gran medida de factores externos directamente relacionados con decisiones del gobierno del estado

esta práctica viene a suponer una imposición de políticas de gestión de plantillas que en puridad

siempre ha defendido que las tasas de reposición contravienen claramente nuestra capacidad de autoorganización lo que de facto supone una erosión competencial

con la mirada puesta en el logro del objetivo que compartimos reducir las tasas de temporalidad

yo escuchándole a usted diría que no hay ningún problema

sería necesario asumir que son tres compromisos básicos que en parte parece que comparte pero no acabo yo de ver esto materializado en ninguna propuesta y hablamos de tres compromisos el primer compromiso es hablar sin vetos y negociar acuerdos sobre los procesos de consolidación del empleo interino y temporal en abusos fraude de ley

a europa estos procesos de consolidación deben de servir también en los términos declarados por las resoluciones judiciales del tribunal de justicia de la unión europea para resarcir la situación de precariedad que vienen soportando

miles de personas empleadas públicas a las que como he dicho antes se les ha negado la opción de consolidar su empleo público y las tasas de reposición es cierto que no han contribuido

entendemos que el problema es anterior por ello

soluciones excepcionales y para ello es necesario poner en marcha procesos de consolidación flexibles mediante concurso oposición con exámenes prácticos

y una valoración máxima de la experiencia de los años de trabajo o incluso también es necesario poner en marcha concursos extraordinarios de méritos en atención a diversas situaciones segundo compromiso hacer un diagnóstico sobre el nuevo empleo público que además es necesario crear esto es

hoy temporal que por su mantenimiento en el tiempo y cobertura de tareas permanentes deba de calificarse como estructural y estamos pensando en miles de trabajadoras

mediante la firma de una cadena de sucesivos contratos temporales estamos pensando también en el empleo público que es necesario crear como consecuencia de la revisión

por ejemplo en el ámbito educativo y sanitario y pensamos que este diagnóstico debe de incluir un plan de relevo generacional que garantice el trasvase de la experiencia

las prejubilaciones y un tercer compromiso revisar y renovar el actual modelo de contratación en la administración pública para evitar que la situación de abuso y fraude en la contratación temporal

y esta es la propuesta de euskal herria bildu para responder a esa demanda sindical que dice enplegu publikoa sortu eta egonkortu y a pesar de sus explicaciones

voluntad para asumir esos tres compromisos y los sindicatos pues parece que tampoco lo han percibido

eta nola ez birjartze tasak desagerrarazteko este gobierno aspira a ser parte de la solución

hemos avanzado medidas serias detalladas planteadas en negociación colectiva y que pretenden dar soluciones reales a la cuestión de la alta tasa de interinidad en la administración en todo caso entendemos que es importante manejar los datos con rigor y en este sentido también es cierto que convendría

sobre las cifras de temporalidad que por parte de algunos agentes se vienen utilizando y que incluyen de manera habitual

así como las contrataciones laborales temporales me parece un ejercicio útil y visual traducirlo a números así por ejemplo en la administración general de euskadi frente a la cifra de tres mil quinientos temporales que barajan algunos agentes la realidad es que las vacantes realmente ofertables

es cierto que no dejan de ser datos preocupantes pero son los datos estos y no otros datos en todo caso que muestran una realidad que es necesario empezar a revertir sin duda

en definitiva y termino vamos a seguir trabajando propuestas de medidas para reducir la temporalidad en el empleo público y más concreto en el desarrollo de los procesos selectivos que faciliten e impulsen la reducción progresiva de la temporalidad apelo a la vía del diálogo y la negociación en la que creo firmemente nuestro compromiso es firme hagámoslo posible eskerrik asko

la sociedad alavesa está francamente preocupada por la invasión de proyectos de megaplantas solares y centrales eólicas en los pueblos alaveses ya son bastantes los colectivos que solicitan paralizar los proyectos

y en los espacios protegidos desde elkarrekin podemos ezker anitza en varias ocasiones hemos planteado la necesidad de una moratoria

regular esta situación hemos podido resultar insistentes en la materia pero creemos que a la vista de las circunstancias y normas ni planes ni zonas de exclusión para los proyectos ni participación pública en la toma de decisiones no existe una justificación para ahora mismo abordar esta cuestión sin todo lo previo cómo justifica señora consejera la instalación de estas megaplantas solares y eólicas

la terminología y la forma en la que se ha expresado esta pregunta probablemente no estaremos de acuerdo en el mismo registro pero no me cabe duda de que tanto usted como yo su grupo como el nuestro está preocupado por el asunto y lo consideramos relevante y al mismo tiempo urgente

y para ello necesitamos acelerar la generación de energía renovable de energía limpia para por una parte dar cumplimiento a las leyes que ya se han aprobado y sobre todo

de ce o dos de gases de efecto invernadero y desde luego aportar en esa lucha contra el cambio climático y para ello necesitamos empezar a trabajar en este momento el pts de energía eólica está plenamente vigente

de energías renovables que permitirá dar un salto cualitativo relevante en cuanto al aprovechamiento de energías y su ubicación más adecuada

de otra tipología de energías renovables pero desde luego lo que no nos podemos permitir es que

para el desarrollo de energías renovables si queremos cumplir desde luego los compromisos adquiridos en esas leyes

zurea da hitza muchas gracias por las explicaciones señora consejera sin duda la justificación de la instalación de estas megaplantas

es compartida pero la cuestión aquí está en el cómo y también en el dónde

estamos a la espera de la autonómica pero en cualquier caso en dicha ley a día de hoy en vigor en el artículo veintiuno

y sobre todo para proyectos de este calado que tienen un impacto importante

en este sentido querríamos saber si en cumplimiento de ese artículo se

las zonas protegidas como zonas de exclusión y luego por otro lado en

comunidades autónomas fomentar asambleas ciudadanas autonómicas que consta

y en este sentido si también en relación con este tipo de instalaciones existe la pretensión de generar dinámicas de participación pública sean mediante

o en su caso mediante alguna alternativa que plantee el gobierno vasco en este sentido porque creemos que la participación pública

cuando se pretenden realizar proyectos de este calado ayer mismo desde nuestro grupo parlamentario registramos sesenta y siete enmiendas a la ley de conservación del patrimonio natural de euskadi

planteamos dos una de ellas prohibir estas instalaciones energéticas pero también otras en espacios naturales protegidos porque consideramos que son zonas de exclusión supongo que eso

en relación al agroganadería o instalaciones de interés público

en concreto creemos que no debiese ser el lugar y no debiese ser el lugar porque existen alternativas creemos que a día de hoy existen cientos de hectáreas en tejados de edificios públicos y privados polígonos industriales aparcamientos

de instrumentos y además comparativamente hablando con otras ciudades o países de nuestro entorno esto ya es una práctica habitual existen estudios de hecho ya en vitoria y también en pamplona que se refieren a que se podría cubrir con este tipo de instrumentos el ochenta y cinco por ciento de la demanda energética no entendemos por qué existe ese empeño por parte del gobierno vasco de instalar megaplantas en zonas

en euskadi o en su caso otras vías de participación ciudadana a la hora de determinar la instalación de este tipo de infraestructuras nos gustaría en ese sentido como ya le digo compartamos estos horizontes y que nos unamos en relación con la tramitación de esta ley en el propósito de que la transición energética se haga no en zonas
protegidas sino en los lugares donde eskerrik asko soto jauna tapia andrea zurea da hitza

señor soto tal como usted decía en este momento estamos tramitando estamos trabajando en la elaboración de la ley de transición energética y cambio climático aquí en euskadi que junto con el pts de energías renovables está además siguiendo

en segundo lugar permítame decirle que cada uno de esos espacios protegidos tiene su propio plan de gestión además que corresponde a las diputaciones forales donde se decide exactamente

de exclusión per se sino que responden a esos planes de gestión en cualquier caso no son megaplantas en euskadi por desgracia no tenemos semejantes

de superficie de ningún tipo para que podamos establecer megaplantas son plantas desde luego como mucho de carácter mediano perfectamente asociadas al territorio en cualquier caso el desarrollo de estos proyectos no conlleva desprotección del territorio ni conlleva ninguna

urbanísticos o territoriales cualquiera de ellos va a cumplir todos esos objetivos además se va a tener en cuenta que se preserven los valores naturales en cada uno los lugares en los que se van a establecer y señalar que como usted bien sabe

además de ambiental la autorización urbanística y la autorización municipal correspondiente por tanto en ningún caso vamos a poner en marcha ninguna actuación que suponga contravenir ninguna de las normas citadas insisto sin embargo que necesitamos proyectos de todos los tipos tal como usted señalaba los tejados en muchas ocasiones tanto de viviendas como de parques tecnológicos o zonas industriales pueden ser utilizadas siempre y cuando

y eso va a suponer la actuación y la mejora en la generación pero sin embargo no son suficientes necesitamos proyectos de dimensiones pequeñas proyectos como ekiola donde además las cooperativas ciudadanas participan directamente pero proyectos de mayores dimensiones dado que

requiere una generación que en este momento no somos capaces de ofrecerle proyectos grandes y proyectos pequeños ubicados en los lugares correspondientes con todas las autorizaciones y las garantías
pero que no haya un pts de energías renovables no puede paralizar nuestra actuación eskerrik asko

azken faseari buruz barrio jauna zurea da hitza sí gracias presidenta buenos días consejera consejeros bien
hace algo más de un mes el catorce de mayo realizaba a la señora consejera

no habrá más control al ejecutivo hasta a finales de septiembre previsiblemente y estamos en un mes muy importante en relación con la negociación de la política agraria común y de la posición de españa y en este caso también de la posición de euskadi

de la confección de la nueva pac supuestamente lo tiene que estar siendo

especial de agricultura también a efectos europeos la confección del plan

de esa conferencia sectorial de agricultura y medio rural previstos para estas fechas o para estos días

diferentes momentos claves en la negociación de la política agraria común

ha dicho esta semana en el congreso que está en contacto con las comunidades autónomas y desde luego a la vista de esta situación

muy importante previsiblemente julio también lo va a ser a todos estos efectos estatales europeos y usted como responsable de agricultura del gobierno vasco nosotros queremos saber en qué momento se encuentra la negociación

hay mucha incertidumbre hay mucha inquietud en el sector agrícola en el sector ganadero en relación con las consecuencias de todo esto y ustedes nos tienen que decir

nada muy novedoso respecto de la última vez que usted y yo debatimos esto en esta cámara se están produciendo reuniones bilaterales en diferentes días mantuvimos una en madrid el quince de abril

pudimos mantener una reunión el día doce de mayo el viceconsejero se reunió con el secretario de estado el secretario general perdón con don fernando miranda para tratar también un poco dónde estaban nuestras solicitudes

este plan estratégico cuáles eran las claves más importantes pero todos los temas asociados al segundo pilar todavía tienen una gran incertidumbre como usted comentaba

era que se pudiera celebrar una conferencia sectorial allá por el once de junio con todas las decisiones adoptadas para lo cual el ministerio nos iba

nuestros requisitos y nuestras mejoras sin embargo dado que no existió un acuerdo en el trílogo no existió un acuerdo en la comisión europea se ha retrasado para poderlo celebrar en julio como usted bien decía veinticuatro y veinticinco se están celebrando reuniones en este momento para desbloquear esos trílogos

habrá reuniones también de lo que es el consejo de ministros y esperamos que ahí se desbloquee definitivamente tal como nos ha transmitido el ministro este pasado lunes que exista ya el acuerdo que nos permita allá

estableciendo sus prioridades podamos ir a esa conferencia sectorial definitiva

quincena pero eso es todo lo que le puedo decir en este momento dado que no tenemos todavía de ninguna certeza acerca de lo que se va a aprobar en estos días

exista ese acuerdo y a partir de ahí deberemos continuar trabajando

el ministro plana ha ido un poco más allá por lo menos ha dicho que tiene informadas a las comunidades autónomas el otro día

en la página del ministerio que presidió por videoconferencia el consejo consultivo de política agrícola para asuntos comunitarios informar a los consejeros del ramo de lo que se celebrará veintiocho veintinueve supongo que la posición que llevará a esa reunión del veintiocho y veintinueve de julio tendrá que ser informada y ustedes les tendrán que dar

o la abstención en relación con algo que tiene que ser ya materializable dentro de muy pocos días la semana que viene

con este tema tan importante y ese sentido daba una sensación

como con los fondos de recuperación que no se sabe nada que hay falta de información que

hay un pacto también de no dar esa información o porque no salga a los medios de comunicación en alguna cuestión pero

el sector está permanentemente preocupado

las referencias y las declaraciones de los máximos responsables de todas las organizaciones agrícolas y ganaderas y en ese sentido eso es lo que pasa que parecía que los plazos además se van alargando y vuelvo a decir

porque estamos delante de un plan estratégico oculto es decir nadie sabe nada o ustedes no nos dicen nada si saben algo de él y si tienen el acuerdo o no acuerdo o adoptado desde luego las medidas que ustedes les han propuesto

de euros de la pac que va a afectar porque además hay más exigencias en relación

y da la impresión de que nadie sabe nada va a haber reducción de fondos y sin embargo va a haber más cultivos va a haber más hectáreas y va a haber más medidas que aplicar y

tapia andream zurea da hitza señor barrio no quisiera

y seguimos en las incertidumbres que teníamos evidentemente el ministerio tiene que acordar con todas las comunidades autónomas lo que es el plan estratégico único sin embargo en cada una de las comunidades vamos a tener una pequeña flexibilidad hasta dónde nos transmite el ministro pero aspectos esenciales como pago redistributivo

cuántas regiones vamos a tener en este momento de las muchísimas que tenemos ahora hasta dónde se va a reducir cómo se va a repartir todavía está sin definir y todavía está sin definir

la propuesta de cada una de las comunidades autónomas lo hemos debatido en multitud de ocasiones en general y en comisiones bilaterales y con ello el ministro tratará de llegar a un acuerdo entiendo en europa y a partir de ahí tendremos que bajar al acuerdo por eso no le puedo decir nada más

sigue existiendo alrededor de eso sin embargo sí es cierto que también las comunidades de la cornisa cantábrica por ejemplo nos hemos unido en tratar de llevar

de exigencias o solicitudes vamos a decirlo no vamos a elevarlo a nivel de exigencia que nos permita tener un tratamiento un poco diferenciado

creemos que estamos facilitando y estamos aportando y desde ese punto de vista también hemos mantenido diversas reuniones todas las cuatro comunidades de la cornisa para desde luego facilitar también esa

en cuanto a lo que tenemos que hacer a partir de ahí insisto veintiocho veintinueve es la próxima semana y confiamos que el mes de julio sea de trabajo intenso para definitivamente poder tener

en el plan estratégico desde el estado español a europa y que nos permita tener un documento definitivo para finales de año por tanto todavía nos quedan seis meses de trabajo intenso
dentro de las comunidades y con nuestros sectores eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta miembros del gobierno señorías señor azpiazu don pedro maría estamos un viernes más

los viernes de economía en este último pleno de control quería

una serie de cuestiones relativas al instituto vasco de finanzas como ya ha podido leer usted y su equipo seguramente en la interpelación que registramos el lunes

el instituto vasco de finanzas como se sabe es un ente público de derecho privado que está adscrito

y que su finalidad fundacional es actuar como instrumento de política financiera y crédito público de euskadi con una serie de características y limitaciones cuando se creó si la memoria no me falla más o menos en dos mil siete era otro tiempo político también en euskadi quedó ahí más o menos no sé si durmiente pero en fin quedó en un segundo plano el instituto vasco de finanzas y de vez en cuando por alguna iniciativa parlamentaria también pues se ha recuperado la idea relativa a disponer de un banco público depende el grupo parlamentario que lo defendiera en cada momento etcétera pero sí que es verdad

digamos una actividad más bien por no decir inexistente pero bueno muy limitada muy limitada muy moderada y que tampoco hemos percibido

una institución de estas características pero bueno el instituto vasco de finanzas recientemente

hemos entendido hemos leído en los medios de comunicación pues hombre hemos visto cuáles son sus funciones

lo que hemos leído últimamente es que el gobierno vasco ha aprobado un decreto por el que ha autorizado al instituto vasco de finanzas a que cree

que en la que un capital ciento sesenta millónes con perspectiva según parece de ampliarlo hasta quizá trescientos millónes esto quizá nos lo pueda usted aclarar y con el objetivo de adquirir enajenar y gestionar participaciones financieras a largo plazo

el arraigo de estas en euskadi y que ejerzan un carácter tractor sobre el conjunto del tejido productivo vasco

a mí como declaración de intenciones pues hombre me puede parecer

pero sí que me surgen una serie de dudas que por eso me gustaría que en este pleno de control más tranquilo

la primera por qué tenemos que tener un instituto vasco de finanzas qué nos aporta qué nos pasaría si no lo tuviéramos

podría el gobierno cumplir con sus funciones si no lo tuviéramos si nos ahorráramos ese gasto se lo digo por la pregunta real que es por qué se crea una empresa nueva es decir si ya tenemos el instituto vasco de finanzas que a su vez depende de su departamento por qué crear otra empresa

directamente desde el departamento cuál es la razón por la cual se produce de nuevo esta huida del derecho administrativo que suelen decir los clásicos

el propio departamento la segunda duda que me surge es la cuestión del arraigo el arraigo en términos de qué lo medimos lo medimos en términos

centro de decisión estratégico lo medimos en términos de empleo local o lo medimos en términos de tributación real y efectiva ese es el tema un poco del arraigo

un poco más el tercer punto que me preocupa es el relativo a qué pretendemos y qué pretende el gobierno al final con este tipo

mantener empresas que a lo mejor están en una situación financiera etcétera delicada y tal

la forma de participar digamos o de entrar en estas empresas va a ser a través de una toma de participación del capital de prestamos etcétera suscripciones ya hemos visto un poco

con toma de una personación ahí en los centros

habrá plan de entrada habrá plan de salida cada cuánto se va a evaluar y sobre todo lo que más me preocupa qué criterios qué criterios

el gobierno para establecer

cuándo entra cuándo sale qué empresas se considera estratégica qué empresa no se considera estratégica y de qué manera

porque lo de entrar puede ser una decisión relativamente sencilla en términos políticos en una situación de crisis y a corto plazo pues la presión política que puede tener cualquier gobierno es lógicamente salvar a corto plazo los empleos locales que puedan depender de esas empresas porque claro esto luego tiene

señor azpiazu que es el tema de qué pasa con estas empresas también a largo plazo si no se consigue que sean competitivas también

pensadas desde una buena intención es que lo coyuntural que pueda ser ayudar o apoyar o prestar músculo financiero a corto plazo a una empresa se pueda convertir en algo recurrente y sobre todo en algo estructural ese es el miedo el miedo que tengo es que acabemos creando una sepi vasca ese es el miedo que tengo

una sociedad de participaciones que no se mueva con criterios económicos que se mueva con unos criterios que sean netamente políticos que es una opción que además hay grupos parlamentarios que aquí lo defienden vamos sin cortarse en los argumentos pero claro yo aquí haría más hincapié en otras cuestiones haría hincapié sobre todo en analizar las razones por las cuales hay empresas que desgraciadamente

cuáles son los problemas reales de competitividad y sobre todo invertiría el dinero en mejorar la competitividad

hacer más competitivo el entorno esa en mi opinión es la clave que yo creo que puede compartir conmigo yo

varios problemas ahora espero que en su contestación pues algo me aclare pero yo veo problemas

la primera de ellas veo un problema claro de competencia

cuando se toma una participación por parte de una entidad pública o me da igual en este caso una empresa de capital cien por ciento público que sería un medio propio

que la propia comisión europea las autoridades nacionales y en su caso

quitando las llamadas técnicamente ayudas de minimis usted sabe que la comisión europea esto lo mira con lupa cualquier tipo de ayuda de estado es un problema que tengamos jurídicos y que atentemos contra la propia seguridad jurídica y nos acabe saliendo más caro el posible remedio

he dicho problemas de competencia en segundo lugar problemas de competitividad también insisto me preocupa que acabemos convirtiendo en estructural algo que tenga que ser coyuntural por eso que me aclarase si con el plan por el cual o la decisión por la cual el gobierno decida

igual que hay un plan de entrada haya un plan de salida y de qué manera se va a estructurar ese plan de salida de la empresa competencia competitividad

estrictamente de control político de control parlamentario porque ya no es que sea el departamento el que gestiona el fondo

ya no es que sea el instituto vasco de finanzas el que gestiona el fondo ya es que es una empresa

y ya estamos en una tercera entidad y me imagino porque con esto al final lo que vamos a hacer señor azpiazu es parlamentarizar una serie de decisiones que tienen que ser en mi opinión mercantiles privadas basadas en criterios y en hechos económicos

aquí al parlamento por todo esto señor azpiazu hoy le planteo esta interpelación que sintéticamente sería

del gobierno y concretamente de su departamento en relación con las actuaciones presentes y futuras del instituto vasco de finanzas y su posición en el entramado institucional y económico de euskadi espero con interés

le quiero tranquilizar le voy a tranquilizar el gobierno va a cumplir la legalidad señor gordillo no se preocupe

que el gobierno los va a cumplir de la propia justificación

en efecto como usted bien describe el instituto vasco de finanzas se crea como un ente público de derecho privado

competente en materia de finanzas por la disposición séptima de la ley quince barra dos mil siete de veintiocho de diciembre por la que se aprueban los presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil ocho con el fin

de la política financiera y de crédito público de la administración de la comunidad autónoma de euskadi nada por tanto que añadir a esa posición ni en relación a su naturaleza ni en relación a su adscripción

no creo que debamos abundar en sus competencias y funciones por considerarlas igualmente conocidas ya le anticipo desde ahora que no hay intención por parte del departamento de la presente legislatura instar al gobierno modificación alguna respecto a la naturaleza y la adscripción citadas

la actividad del instituto vasco no fue muy intensa como usted ha señalado

y de su participación en el marco del programa para la realización de inversiones científico tecnológicas en la comunidad autónoma del país vasco

cuando se incrementó notablemente la actividad del ente básicamente la de naturaleza crediticia

y más en concreto con la puesta en marcha en dos mil catorce de diferentes líneas de actuación financiera a pequeñas y medianas empresas personas empresarias individuales y profesionales

a la exportación para pequeñas y medianas empresas en consonancia con el plan de internacionalización empresarial a centros tecnológicos y centros de investigación cooperativa a pequeñas y medianas empresas y empresas de mediana capitalización y a empresas de los sectores agrario forestal pesquero alimentario y desarrollo rural

bideratu zituen durante la presente legislatura además de mantener las ya existentes el instituto vasco de finanzas puso en marcha nuevas líneas de financiación señaladamente líneas de circulante en los

e innovación el programa de apoyo para las empresas que pueden verse afectadas por el brexit el programa aurrera de apoyo a emprendedores y nuevas empresas y el programa nekafin

en esa undécima legislatura es cuando se inicia una profunda reflexión para proceder a la racionalización de los instrumentos financieros de los que dispone el gobierno vasco para su intervención pública de esa reflexión de la documentación redactada para ayudar en la misma así como de algunos hitos llevados a cabo

ya tiene este parlamento cumplida información a través de las iniciativas oportunas que supongo

procedente profundizar en este momento es precisamente en el marco de la racionalización de los instrumentos financieros públicos

la incorporación a patrimonio empresarial del instituto vasco de finanzas la participación que la administración de la comunidad autónoma poseía en diferentes sociedades como ekarpen

y se procede a una nueva ordenación de la política financiera del gobierno vasco enfocada

y a favorecer el desarrollo de proyectos industriales estratégicos en dicho marco al instituto vasco de finanzas le corresponde desarrollar

ostentar las participaciones financieras del gobierno en los diversos fondos y sociedades gestionar los instrumentos financieros ligados a políticas de gobierno prestamos anticipos

su actividad crediticia en operaciones entre dos y cinco millónes de euros siguiendo estrategias de coinversión con las entidades financieras finantza politikaren

con la creación de una nueva entidad de capital riesgo con el fin de invertir en empresas con necesidad de expansión y transformación mediante la innovación y la internacionalización un vehículo resultado de la colaboración público privada a tales efectos en diciembre del año dos mil nueve el gobierno autoriza al instituto vasco de finanzas participar con doce millónes de euros el nuevo fondo público privado

cuyo objetivo principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de pequeñas y medianas empresas con gran potencial de crecimiento proyección internacional y basadas en una ventaja competitiva fuerte y sostenible

tengan capacidad de arrastre sobre el tejido industrial del entorno y por otro lado mediante la disposición adicional duodécima de la ley trece barra dos mil diecinueve de veintisiete de diciembre

se crea como usted bien ha explicado el fondo estratégico de participaciones financieras finkatuz como dotación diferenciada en los presupuestos del instituto vasco de finanzas destinada a la participación financiera a lo largo a largo plazo perdón

para garantizar que dichas empresas mantengan su arraigo y ejerzan su carácter tractor sobre el conjunto del tejido productivo vasco

tal y como se prevé en dicha disposición la instrumentación

de manera directa por parte del instituto vasco de finanzas o de una manera indirecta a través de una sociedad anónima de capital íntegramente público y titularidad de dicho ente cuyo objetivo será la adquisición enajenación y gestión de las referidas participaciones financieras este es un instrumento que se ha generado de esta manera por un tema operativo y de funcionamiento a estos efectos mediante el decreto ciento veinticuatro barra dos mil veintiuno de trece de abril se ha autorizado al instituto vasco de finanzas la creación de la sociedad pública finkatze kapitala finkatuz sociedad anónima con un capital social fundacional de ciento sesenta millónes de euros y en el marco de la puesta en marcha de la nueva sociedad

podrían ser susceptibles de incorporarse a la nueva sociedad una vez esta se haya constituido formalmente por tanto tanto la adquisición del uno coma veinticuatro por ciento del capital de caf quince millónes de euros como usted también conoce

por seis coma seis millónes de euros estas adquisiciones

de una política financiera para contribuir al crecimiento y arraigo de empresas en el país vasco nire lehen zati hau amaitzeko gogorarazi nahi dut

eta fiskala erabiltzen jarraitzea cómo lo haremos pues a través de la evolución

canalizando e instrumentado las políticas públicas que utilicen instrumentos financieros

avales líneas de crédito y participando en el capital de las empresas que consideran para procurar su arraigo en euskadi estos son por tanto los propósitos del gobierno vasco

y su posición en el entramado institucional y económico de euskadi

muchas gracias presidenta y gracias señor azpiazu lo que ha contado ha sido interesante pero ya lo sabíamos

que tenemos racionalizado que en la primera intervención del gobierno no dé nada nuevo yo le agradezco el resumen que nos ha hecho ha sido muy interesante y revelador y nos ayuda a repasarlo pero

a los propósitos en cuanto se las he reformulado en forma de preguntas pero vamos es decir

por qué se crea una empresa nueva es decir por qué no se hace directamente desde el instituto vasco de finanzas esa es la pregunta en un momento dado usted en su intervención ha dicho no ha sido por una cuestión instrumental pero qué cuestión instrumental

en segundo lugar me parece bien evidentemente que se fomente la competitividad de las empresas que en un momento determinado se analice qué empresas pueden tener viabilidad y

pero por qué hay que hacer una toma de participación en las empresas por qué no ayudarles con avales con prestamos por qué también se ha deslizado otra cosa y es que parece ser que las intervenciones del instituto vasco de finanzas van a ser de acuerdo con algún banco

alguna conexión especial pero también yo creo que los bancos tienen que tener

o sea por lo que ha dicho la verdad es que me acaba confirmando

en el que tengamos ahí una sociedad de participaciones industriales que se queda apalancada

que era ayudándoles a volver a ser competitivas ayudándoles a internacionalizarse y sobretodo

creando y fomentando realmente un entorno competitivo para que estas se pudieran desarrollar

a mí lo que me interesa es mi pregunta es por qué un gobierno

otra vez en un agente económico en cuanto tal

insistir a los estados miembros desde el principio que dejaran de hacerlo que dejaran de hacer este tipo de cosas y prácticamente se había conseguido pero es que todavía estamos viviendo las consecuencias del último proceso

me preocupa que empecemos otra vez con la misma historia es decir no entiendo hombre a lo mejor es verdad lo que llevan diciendo que es que finalmente sean estos socialdemócratas sean demócratas cristianos o social demócratas

mucho más directa como agentes económicos pero no es que esa no sea la tendencia es que esto sí que puede crear problemas realmente

no cabe establecer este tipo de historias de ayudas de estado indirectas y demás yo por eso quizá en el segundo turno el suyo que siempre suele ser mucho más interesante

creo que son ocho trabajadores ocho o nueve trabajadores y un alto cargo no puede hacerlo

qué es lo que entendemos por arraigo realmente qué tipo

haber una toma de accionariado pero ha valorado el gobierno hacer otro tipo de intervenciones sobre todo

o contribuyendo con planes de formación etcétera o ayudando a abrir vías internacionales a estas empresas para internacionalizarlas y hacerlas quizá más fuertes frente a posibles situaciones contracíclicas

en nuestra comunidad y en españa y sobre todo lo más importante qué criterios

si me va a decir que estratégicas hombre iba a decir que no estratégicas pero que ayuden como políticas tractoras tal pero concréteme un poco más

qué es lo que va a entender el gobierno como empresa estratégica muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna azpiazu jauna zurea da hitza

instituto vasco de finanzas opere adecuadamente como nosotros pensamos

del ivf no se preocupe por los temas europeos que vamos a cumplir la legislación europea

evidentemente europeo hay dos cuestiones que han quedado en el tintero a la hora de realizar el recorrido histórico del ivf y sus perspectivas de futuro de las que me gustaría profundizar creo que aclarará bastantes cuestiones

de algún modo han sido puestas en conocimiento de la comisión que usted preside en las comparecencias ante la comisión de economía hacienda y presupuestos los pasados veintiuno de octubre y veintiuno de diciembre con ocasión respectivamente de la exposición de las líneas generales de la actuación en la decimosegunda legislatura del departamento que dirijo

con la primera de ellas pretendo satisfacer su inquietud respecto al papel que haya

en los próximos tiempos y los derroteros por los que se moverán las adquisiciones de capital en los que participe para el arraigo empresarial vasco y el aporte de lo público para ello también la relación entre la sociedad y el propio vf ha de ser mencionado y como ya se lo he mencionado también

e inscripción en el registro mercantil de la sociedad recientemente autorizada por el consejo de gobierno proceso que está a punto de concluir tras la revisión y adecuación a la legalidad de los estatutos societarios propuestos

los criterios de inversión y desinversión así como las pautas para la participación en los órganos sociales y para la adopción de los acuerdos en las sociedades participadas

estos entre los principios rectores criterios y pautas de la actuación en la gestión de las participaciones financieras de fondo que se han aprobado

así como a la normativa europea aplicable en materia de ayudas de estado también estarán disponibles en la página web y en el portal de transparencia del instituto vasco de finanzas

trece barra dos mil diecinueve de veintisiete de diciembre por la que se aprueban los presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi para el ejercicio dos mil veinte

cuando se inscriba la constitución de la sociedad

apruebe los estatutos y su contenido por último

a la comisión de hacienda y presupuestos del parlamento vasco de las operaciones realizadas con cargo a las dotaciones de dicho fondo en el plazo de tres meses desde que se produzcan y publicará también una memoria anual sobre la gestión del mismo laburbilduz erabateko gardentasuna sozietate horren jarduerari dagokionez

no tratada en mi primera intervención pero que también es conocida y es la intención

un proyecto de ley específico el tratamiento completo sin cambiar la naturaleza y adscripción del instituto vasco de finanzas de los nuevos fines nuevas funciones y nuevos procedimientos de intervención pública mediante los instrumentos financieros de los que

haciendo evolucionar como en alguna otra ocasión he señalado al actual instituto vasco de finanzas a que por lo menos se convierta en un instituto de crédito público vasco para la financiación de las políticas sectoriales del gobierno vasco hoy

gracias señora presidenta señor fernandez de betoño no existe una decisión

necesiten de una solución provisional no soterrada el soterramiento del tren de alta velocidad en vitoria y bilbao no se ha cuestionado en ningún momento

trabajamos para que sea una realidad lo que ha habido es una reflexión por mi parte

los soterramientos con la puesta en marcha del servicio habida cuenta de que los tiempos de finalización de las obras de la red principal y de las integraciones urbanas pudieran

lo que yo he planteado es algo muy sencillo de entender y no significa

le repito que todas las instituciones implicadas tanto el gobierno vasco como el gobierno de españa los ayuntamientos y las diputaciones

estamos comprometidas con el soterramiento del ferrocarril en bilbao y en vitoria gasteiz

fíjese si estamos comprometidos con el soterramiento en el gobierno vasco que vamos a pagar el veinticinco por ciento de su coste en las dos ciudades como ya he comentado en varias ocasiones el horizonte planteado por el gobierno de españa para la finalización de las obras del ramal principal de la y vasca

mientras que a día de hoy los accesos a bilbao y vitoria están todavía en fase de tramitación de estudio informativo mi interés como consejero de transportes es que todas las obras avancen de la manera más ágil posible pero también que el tren de alta velocidad se ponga en servicio lo antes posible y en ello estoy poniendo mi empeño

que según las previsiones finalizaremos en esta legislatura pero también en los accesos a vitoria gasteiz y bilbao

a la tramitación de sus estudios informativos ya lo estamos haciendo en vitoria con la licitación de la redacción del proyecto básico prevista para después del verano

y que se plasmen y firmen en un protocolo de compromisos incluidos los financieros compromiso de todas las instituciones que tenemos interés en participar en el proyecto

y nosotros estamos de acuerdo este protocolo siguiendo el modelo alavés sería el paso previo para la constitución de la sociedad que se encargará del soterramiento en bilbao

señor fernandez de betoño esta es una obra muy compleja larga y no exenta de dificultades evidentemente

realmente me sorprende su interés y de su grupo por una infraestructura que han denostado públicamente e intentado paralizar desde un principio si fuera por ustedes en euskadi no habría tren de alta velocidad y por lo tanto tampoco habría necesidad de acometer su integración en bilbao y en vitoria

y con el resto de españa en todo caso y ya que le veo tan preocupado con el tav

y pedir a los ayuntamientos gobernados por eh bildu que intenten no poner tantas trabas administrativas

por facilitar el desarrollo de las obras porque evidentemente

eskerrik asko señor arriola el pasado quince de diciembre el gobierno vasco compró catorce viviendas al obispado de bilbao por uno coma siete millónes de euros cinco meses después el catorce de abril

una carta una demanda de desahucio la demanda la presentó el obispado de bilbao carlos

únicamente cuando esta falleció con su hermana en la única vivienda que el gobierno vasco no compró al obispado de bilbao

que tanto el obispado tiene un compromiso teórico con los derechos humanos y el departamento de vivienda tiene un compromiso legal a través de la constitución y de la ley de vivienda con la satisfacción de derecho de vivienda a los ciudadanos

como usted señala en la justificación donde se pregunta el gobierno vasco

todas ellas vacías sin inquilinos este tipo de operaciones

incorporando pisos vacíos e incrementando así las posibilidades de acceso de las personas que demandan un alquiler asequible a través de las listas de

la vivienda a la que usted hace referencia no ha sido ofertada en ningún momento al departamento de planificación territorial vivienda y transportes y nadie

se han puesto en contacto con nosotros para abordar la situación de ese posible desahucio eskerrik asko arriola jauna martínez

perplejo y preocupado e indignado con su respuesta sí lo sé yo qué no se sabrá el departamento de vivienda sobre lo que está pasando en ese bloque carlos griano tiene un hogar tiene una vivienda en la que vive desde hace sesenta y uno años como decía primero con su madre

esa persona allí y esa vivienda se ha quedado fuera de esa compra por parte del gobierno vasco de un lote completo del obispado de bilbao

le quería hacer algunas reflexiones el obispado tenía esas viviendas vacías desde hace más de diez años incumpliendo su función social establecida en la constitución y establecida en la ley de vivienda

por canon de vivienda vacía el convenio que usted el departamento tiene firmado con el gobierno vasco para perdón con el obispado para movilizar vivienda

de alokabide yo le pregunto por qué no se ha hecho así en esta ocasión era mejor la compra a precio tasado de una herencia por la cual el obispado de bilbao ha ganado el cien por ciento

a cumplir la función social de la vivienda mediante su movilización para el alquiler y lo que ya duele preocupa indigna y me parece totalmente fuera de lugar es que se haya dejado esa vivienda fuera de esa compra la única

la única vivienda además que cumplía y que cumple la función social de la vivienda en este caso sigue siendo propiedad de la iglesia y su usuario

social yo le hago una propuesta ya que no quieren rectificar dejar fuera a esta vivienda de esa compra convoque una reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento que tiene ese acuerdo que tienen con el obispado para convencer al obispado de que retire demanda y para buscarle una solución urgente que para nosotros ahora mismo es que carlos se quede en su casa no hay derecho a la iglesia y no sabemos si ha habido mala fe por parte

no sabemos si en el vamos que no hay derecho a que la iglesia haga esto que ponga una demanda de desahucio y que el gobierno no actúe

esta misma mañana le hemos enviado una carta al señor obispo a joseba segura para que retire esa demanda usted como consejero de vivienda tiene que actuar evitar este desahucio que se ve en mitad de una operación de compra por parte del gobierno vasco

de compra la vista es el día quince de julio y por tanto yo creo que es momento de hacer más caso a curas obreros como periko salaberria y dejar dormir tranquilo y dejar soñar tranquilo a carlos y disfrutar de su derecho a la vivienda digna en su vivienda desde hace más de sesenta años gracias

arriola jauna zurea da hitza señor martínez como consecuencia de la decisión que se adoptó por parte del departamento de compra de esas viviendas
hay catorce viviendas más del parque público de vivienda que se destinan a alquiler social

y le he dicho al principio y quiero que quede claro que esa vivienda nunca ha sido objeto de oferta por parte del obispado

también creo que usted es consciente de ello porque no es la primera vez que pregunta por el tema y desde el departamento se le ha trasladado puntualmente toda la información de la que disponemos

plantea nuestro departamento gestiona en la actualidad quince mil ochenta y nueve viviendas en régimen de alquiler un número muy significativo

en nada menos que un veinticinco por ciento en los últimos cuatro años pero que sigue siendo insuficiente para atender a toda la demanda existente y en este sentido seguimos trabajando en diferentes líneas de actuación que nos ayuden a ampliar tanto el parque público de alquiler

del resto de administraciones públicas especialmente de los ayuntamientos así como de otros agentes económicos y sociales públicos y privados

pero más allá de estas cuestiones directamente relacionadas con nuestro quehacer diario

con el que este departamento está implicado desde hace mucho tiempo el de buscar soluciones para las personas deudoras de buena fe que se ven abocadas a un desahucio tanto por ejecuciones hipotecarias como por impago de alquileres desde dos mil trece funciona en euskadi un convenio de colaboración entre el consejo general del poder judicial

este convenio se reformó y actualizó en dos mil diecinueve y su objetivo es detectar supuestos de vulnerabilidad en los lanzamientos y posibilitar tras el análisis de los servicios sociales municipales la adopción de las medidas de carácter social que correspondan

estas pueden darse en forma de vivienda pero también de prestaciones económicas o de otro tipo de asistencia de momento

no ha llegado a ese límite por lo que hemos leído los canales de comunicación todavía siguen abiertos entre el propietario y el inquilino

para ambas partes si lamentablemente no fuera así será en el marco del convenio al que

en el que se deberá de abordar su situación al igual que hacemos con el resto de personas en situación de vulnerabilidad eskerrik asko

más plazas tanto para el personal médico como para el personal de enfermería más inversión en equipamientos e infraestructuras sanitarias y nuevas medidas organizativas llevamos tiempo aquí como para saber que todos los veranos se produce una reducción de la demanda de consultas de atención primaria del orden del treinta y tres por ciento

que desde la obligación de la gestión responsable y adecuada de los recursos públicos no podemos ignorar como tampoco podemos ignorar que los profesionales de la atención sanitaria necesitan descanso tras un año y medio

tampoco desconocemos que hay que mantener el ritmo de vacunación durante el verano para adquirir el mayor nivel de inmunidad de la sociedad y finalmente

algún tiempo la demanda de personal facultativo y de enfermería de osakidetza es superior

en algunas especialidades no hay personal de medicina y enfermería suficiente en esos casos para cubrir las plazas que ofertamos pero no las amortizamos las mantenemos ofertadas luego no hay ninguna reducción hemos incorporado a muchas personas de fuera de euskadi a muchas y aun así no sigue siendo suficiente y no se trata de un problema económico ya les he explicado en la presentación del presupuesto de este año cuál era el incremento de la partida destinada a osakidetza y en especial a la lucha contra la covid no se puede

pretender que los ingresos de personas afectadas por covid no alteren la actividad normal de los hospitales que las listas de espera no aumenten que la atención presencial se haya reducido no se puede pedir que se dé descanso en verano a los profesionales y pretender

en este caso durante el verano si no ha quedado claro lo explico nuevamente durante el verano pues bien con todos estos inconvenientes

hasta alcanzar un equilibrio entre la demanda de la ciudadanía y la oferta que está en estos momentos vigente en la situación epidémica en la que nos encontramos todavía la ciudadanía está exigiendo una atención no presencial de manera importante hasta el punto de que nos obliga en algunas ocasiones a reconvertir citas presenciales y no presenciales para dar respuesta a su demanda el inicio de las vacaciones una modificación al respecto seguiremos realizando seguimiento y ampliando las ofertas de dichas consultas donde así se requiera sí es cierto

es más complicado porque hay todavía hoy que continuar con la sectorización pero a pesar de ello se está incrementando la presencialidad

con las reorganizaciones temporales que tenemos previstas el nivel de servicio al de veranos anteriores puede que no idéntico a lo que se ha hecho otros años en cada consultorio y en cada ambulatorio pero sí con el mismo nivel de atención

nunca ha cerrado sus consultas ni ha dejado de atender a la ciudadanía simplemente se ha adaptado para dar la mejor respuesta posible en cada uno de los escenarios

la necesaria adecuación de los servicios de verano provocada por la reducción de la demanda con el futuro de la atención primaria gogorarazten dizut

aukerak denak izaten dituztela y además en la ampliación del personal de atención primaria en

en relación a las infraestructuras este año hemos inaugurado los centros de irala aiete

laudio y se ha acordado su ubicación pero no son únicas esas actuaciones además tenemos previsto modernizar e instalar ascensores en los centros de salud de gros errenteria zuazo derio ondarroa reformar los centros de salud de areta eibar deusto markonzaga kabiezes bergara tolosa ordizia laudio

casco viejo de vitoria gasteiz y en el ámbito asistencial hemos elaborado ya lo hemos hecho hemos elaborado

e inversiones inversiones en materiales destacar que ya y es así lehen arreta cincuenta ecógrafos veinticinco ecógrafos ultraportátiles quince espirómetros ciento treinta y cinco dermatoscopios veinte torres de contraste integradas ciento cuarenta autoclaves y doscientos cuarenta y uno

todo ello redunda en la atención primaria eta zergatik pertsona erdian daukagulako baina bukatuko dut

un setenta y siete por ciento un doce por ciento con un aprobado y solo el cinco le otorgaba el suspenso no será entonces

un tema que nos parece muy importante es el tema del suicidio ayer mismo de mano del debate que hubo sobre salud mental tuvo numerosas referencias parece cada vez que ocupa más no solamente

a la sociedad y por supuesto a nosotros porque cada suicidio como todos sabemos supone una tremenda tragedia personal y familiar

de silencio de tabú que dificulta que la sociedad tenga una conciencia

consideramos que cada suicidio es un fracaso de toda la sociedad y por tanto que es responsabilidad de las instituciones poner en marcha todos los mecanismos posibles para intentar evitar todos y cada uno de ellos

oms publicadas hace pocos días en dos mil diecinueve se suicidaron

lo que significa que uno de cada cien muertes es debida

más que las muertes provocadas por guerras sida paludismo o cáncer es un dato que a veces no somos conciencia de la importancia que tiene

y supera al número de víctimas de homicidios accidentes de tráfico y violencia de género juntas ciento ochenta y siete ciudadanos vascos se quitaron la vida en dos mil veinte uno cada dos días de media lo que representa un preocupante incremento del veintisiete coma dos por ciento respecto al año anterior

que lógicamente ha incidido en esta cuestión pero esto no nos puede hacer

ni considerarlo aceptable cada una de las muertes es importante y por eso señora consejera hoy le pregunto cuál es la valoración del ejecutivo

es que aún no se puede utilizar el dato anual como único indicador de la evolución de la incidencia y de la utilidad de la estrategia aprobada en el dos mil diecinueve porque al ser un número total pequeño cualquier incremento o disminución reflejaría variaciones porcentuales muy altas si hiciéramos

debería decirle que los suicidios que han sido contabilizados entre el uno de enero y el treinta y uno de mayo de este año

y en ese caso la valoración sería positiva pero no no voy a hacer ese ejercicio no porque creo que no es en esos términos en los que ha de hacerse esa valoración y porque evidentemente todas y cada una de las vidas perdidas

en absoluto con estos datos culpabilizarle a usted

obvio que es un fracaso de toda la sociedad y es verdad lo que usted dice de que efectivamente

cambia mucho pero es cierto que es un tema que tenemos que prestar mucha atención y más especialmente en este momento

muy preocupante ustedes presentaron una estrategia de prevención del suicidio en dos mil diecinueve

y sí que queremos pedirle señora consejera que el gobierno vasco haga lo que esté en su mano se ponga las pilas con esto

la cifra del suicidio evalúe todas la estrategia pero sí que es verdad que

todas y cada una de estas muertes porque no es aceptable

la apuesta por la salud mental y el tema de suicidio yo creo que va incluso un poco incluso más allá

es fundamental y especialmente en las etapas infantiles porque influyen decisivamente en la salud mental adulta y ahí tenemos un gran problema de salud pública

consideramos que no caben posiciones partidistas y sin duda tampoco ideológicas por eso

le pregunto en qué podemos ayudarle qué podemos hacer

para trabajar en este tema porque consideramos que cada vida que se pierde se pierde un tesoro

y que además la sociedad parece que no lo quiere ver o que no lo vemos con la fuerza que tiene realmente

es que esto tenga la visibilidad que necesita por eso una de las cosas que seguramente habría que hacer es concienciar a la opinión pública sobre la importancia de este asunto

tratamiento pero eso no quita para que hagamos todo lo posible yo

y esto es lo que me preocupa en ese sentido repito

todo lo que sea posible y ofrecer nuestra colaboración al respecto gracias eskerrik asko gil jauna sagardui andrea le agradezco señor gil tanto su ofrecimiento

a colaborar estoy segura que con esa intención podremos hacerlo es cierto que no sabemos cómo va a ser la evolución

no podríamos saberlo como hablábamos antes porque la incidencia

nada significativas verdad pero sí es cierto también y usted me decía qué medidas que aún no se han adoptado que la estrategia

del suicidio en euskadi establecía unas medidas a medio

ya estaba así previsto en la propia estrategia sabe que se están trabajando en el establecimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica que nos sirva

suicidios consumados y se establezcan las relaciones entre ellos porque entre otras cosas y lo ha mencionado usted no solo la salud mental es el único detonante de esas decisiones pensamos que con ello se puede llevar a una contabilización de muertes por suicidio mente para también poder mejorar la precisión y la precisión de las medidas además ya se está trabajando en la contextualización de áreas o entornos

tras ese proceso vendrá la aplicación de medidas pasivas de control y disuasión pensamos que con eso podemos tal vez entender mejor cuál es la causa

y además de la contabilización y registro de los intentos de suicidio es esencial para evitar riesgos de suicidio a futuro esto es ir por delante no hablar ya de los que se o las que se han suicidado sino de aquellos que han mostrado un intento

un acompañamiento de hecho desde osakidetza se está trabajando

que procurará un seguimiento cercano de las personas que acudan a la urgencia hospitalaria por un intento de suicidio en colaboración con el resto también de la red de salud mental también de la atención primaria también

además de esas medidas coincido totalmente con usted que tenemos que hacer una atención a los supervivientes la formación y la sensibilización del sistema comunitario

educativo yo creo que es lo que nos va a ayudar a esa detección precoz y por lo tanto a tratar de poder ayudar a esas personas que se encuentran en una situación tan crítica con diversos motivos como que deciden hacer de su vida

nadie deseado que es el del suicidio espero que entre todos y todas lo consigamos eskerrik asko

el objetivo del instituto gogora es promover la configuración de la memoria de forma inclusiva y garantizando la participación ciudadana pero la expresión de pluralismo en la configuración de la memoria tiene un límite

la memoria tampoco puede ser utilizada para legitimar ningún terrorismo o conculcación de derechos dicho esto un breve vistazo a las actividades y noticias de la institución dejan claro que su trabajo no es este que no se respetan los estatutos

muchos asuntos relacionados con la memoria hechos que según ustedes no merecen ni una sola mención

y deja cuarenta y cinco heridos uno de los atentados más graves de la historia de españa

ya vivíamos en democracia ni una sola mención en gogora no es un hecho significativo de nuestra democracia veintiuno de junio del noventa y tres

al teniente coronel del ejército del aire josé alberto carretero

al teniente coronel del ejército de tierra fidel dávila garijo

domingo olivo esparza el funcionario civil del ministerio de defensa pedro robles lópez que conducía por supuesto el vehículo y el teniente coronel del ejército del aire juan romero álvarez además cuarenta personas

incluidos entre ellos tres niños ya vivíamos en democracia ni una sola mención en gogora no está el ejército entre los garantes de nuestra democracia veintidos de junio del setenta y siete a javier de ybarra y bergé

le matan no fue un civil del mundo editorial asesinado por una organización política eta en nuestro territorio veintidos de junio del setenta y nueve francisco

no fue un civil asesinado en democracia por motivos políticos veinticuatro de junio del ochenta y uno ignacio ibarguchi y los hermanos juan manuel y pedro conrado martínez castaños eran tres vascos que eta confundió con tres agentes de policía

ni mención por parte de gogora no son la demostración de cómo se vivía aquí por culpa de la organización terrorista eta no son tan víctimas de primera como por ejemplo

y otros tantos más que por motivo de tiempo no puedo incluir sin embargo qué encontramos en su web

asesinados por la policía denuncian el resto de violencias que vox por supuesto también condenamos pero tienden a olvidar la mayor anomalía de nuestra democracia la historia de eta y sus más de ochocientos víctimas mortales con ello consiguen lo que precisamente dicen querer evitar homologarlo todo

por lo tanto visto los criterios de su instituto más que de memoria creemos poder decir que es de propaganda

los criterios de la institución para que podamos considerarlo de algún otro modo eskerrik asko martínez andrea artolazabal andrea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea señora martínez le voy a hacer una recomendación que de verdad
sin ningún tipo de acritud léase bien el texto de la ley cuatro barra dos mil catorce de creación de gogora y léase sus planes cuatrienales hablan de memoria crítica

de memoria inclusiva hablan de memoria para la convivencia hablan de memoria de las víctimas de verdad al servicio de la verdad al servicio de la restauración

y estos son los principios que inspiran los planes de actuación de gogora también el plan que hemos presentado hace poco el plan veintiuno veinticuatro

ahondando en la convivencia su pregunta es genérica usted no me decía si se refería a la memoria histórica a la memoria reciente

y voy a intentar contestarle sí el pasado sábado participamos junto con otras instituciones y organizaciones y entidades en el acto de homenaje a los gudaris y milicianos asesinados en el monte artxanda días antes de la toma de bilbao

a las familias que han visto reconocido su derecho a exhumar los cadáveres inhumados en el valle de los caídos y también le digo con sano orgullo que hemos creado en gogora una base de datos con

víctimas señora martínez de todos los bandos y se refiere a memoria reciente si se refiere usted a la memoria reciente como es lo único que

en su interpelación el lunes de la semana pasada homenajeamos

policial en el cincuenta y uno aniversario de su muerte por la guardia civil y mañana veintiséis de junio día internacional de apoyo a las víctimas de la tortura instaurado por la asamblea general de naciones unidas entregaremos

a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política porque restaurar la dignidad restaurar la verdad es un derecho y un deber

es imprescindible e inalienable y me ha visto a usted y a mi equipo

trabajando colaborativamente con sus asociaciones y fundaciones participando en sus actividades programas jornadas y seminarios

pero le confirmo que nunca voy a utilizar a las víctimas a ninguna víctima y por supuesto tampoco a las víctimas del terrorismo de eta

los concejales y los cargos públicos amenazados por eta ya

en este caso sobre el sufrimiento padecido por los funcionarios de prisiones por el injusto terrorismo de eta y

en el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo organizado por el congreso de los diputados en madrid para mí todas las víctimas son iguales
más que víctimas de primera y espero que para usted también señora martínez eskerrik asko artolazabal andrea martínez andreak hitza hartu behar du ez

gracias presidenta buenos días de nuevo a todos y todas consejero consejera señorías

yo no me quiero extender mucho en esta parte pretendo conocer lo que se va a hacer y quiero hablar del camino de santiago

y del apoyo institucional el camino de santiago como todos ustedes saben ha recibido numerosas distinciones internacionales por

su consideración como bien de interés cultural convertirse en el primer itinerario cultural europeo

muchos otorgados por el consejo de europa ya en mil novecientos ochenta y siete y muchos más uno de los reconocimientos más importantes de la historia del camino de santiago tuvo su lugar en mil novecientos noventa y tres cuando la unesco lo declaró

dos rutas además en ese camino también tenemos

también podrá hacer cosas en relación con potenciar el valor patrimonial de esta ruta como decía antes euskadi es una

por la que discurren dos rutas del camino de santiago el camino de la costa y el camino del interior

el de san adrián y además yo creo que

de esta interpelación es por varias cuestiones la primera porque estamos en pleno año xacobeo dos mil veintiuno además

anunció tras la apertura de la puerta santa que el año santo se prolongará

es una magnífica noticia y además es que comienza

estos dos años una década jacobea que vamos a disfrutar

de más años santos compostelanos en dos mil veintisiete sin ir más lejos

diez años y donde si las actuaciones son buenas en la promoción

entidades públicas en relación con el camino son buenas y acertadas todos nos vamos a beneficiar y se va a beneficiar esa ruta

turística y se va a beneficiar y nos vamos a beneficiar todos por el atractivo que tiene a su paso por esta comunidad autónoma como por otras recientemente también hemos visto otras noticias que tienen que ver con la dimensión de lo que nosotros pretendemos qué se va a hacer en el país vasco hemos visto que el ejecutivo central ha presentado el viernes precisamente el viernes pasado en oviedo el plan nacional

que es un proyecto para impulsar los caminos de santiago como producto cultural patrimonial la inversión es de ciento veintiuno millónes de euros que supuestamente se financiará con los fondos europeos next generation

y además en el caso de euskadi en este plan nacional turístico xacobeo euskadi el proyecto contempla intervenciones

en esa materia en patrimonio histórico del país vasco por un importe total de cinco coma cinco millónes de euros en un total de dieciséis espacios identificados y no voy a decir ahora yo creo que es necesario seguir actuando en lo patrimonial en lo artístico en lo

y la intervención del gobierno central ahí está será suponemos en colaboración y

a partir de esta situación también queremos saber la dimensión vasca de las actuaciones que va a abordar

tiene que ser así pensamos que es importante tiene que haber una dimensión vasca del tratamiento un plan

con el camino de santiago con los caminos de santiago y se necesita un plan específico también para revitalizarlo para impulsarlo para fomentarlo aprovechando además ahora la celebración de ese año santo que se prolongará a dos mil veintidós

fundamental para convertir el camino en un producto podemos decirlo estrella dentro de lo turístico en aquel momento

y ha añadido ese valor turístico al resto de valores artísticos culturales históricos

las pretensiones o los propósitos del gobierno vasco en relación con potenciar ese camino

atribuidas al camino de santiago en los presupuestos del departamento de cultura

hemos visto también los contratos en relación con algunas cuestiones que

pensamos que es necesario un impulso no hemos visto se ha hecho se ha anunciado por parte del gobierno central para toda la parte para todos los caminos de santiago en españa y ese plan incorpora medidas para conservar y hacer un mejor uso de los caminos y para impulsar la actividad turística y económica se trata de un proyecto muy importante y con una dimensión cultural

internacional de carácter internacional y vuelvo a decir tenemos la fortuna de tener dos caminos

como elementos de referencia entonces nuestro

del año que vivimos a la vista de los planes que tienen otras administraciones saber

con el desarrollo conservación y difusión del camino de santiago de los caminos a su paso

el camino de santiago es uno de los elementos patrimoniales y culturales más relevantes y universales con que cuenta europa

es también un bien cultural vasco de referencia el camino como bien ha dicho fue declarado conjunto

y luego ha tenido posteriores reconocimientos por parte del consejo europeo y también por parte de la unesco que lo calificó como patrimonio de la humanidad según la unesco hay más de mil ochocientos edificios religiosos y civiles de interés

y está considerada como una de las rutas más importantes de la cristiandad medieval junto con las que iban a jerusalén o a roma por tanto un patrimonio cultural en el más amplio sentido de la palabra por un lado por el camino físico en sí y por la cantidad de bienes culturales materiales que se hallan en todo su recorrido y por otro por el patrimonio inmaterial que la antiquísima tradición de la peregrinación representa habría que sumar también a ello el recurso que se ha convertido tanto para la práctica del turismo cultural el descanso espiritual la actividad física o para la relación entre pueblos culturas e idiomas el camino de santiago lleva años siendo un fenómeno social creciente la pandemia

al que se enfrenta esta en este nuevo episodio si atendemos a los datos de los últimos años por ejemplo el

ofrece la siguiente fotografía el año dos mil dieciséis llegaron

el dieciocho siete mil ochocientos y el diecinueve

a estas habría que sumar un cincuenta por ciento más de personas que según las estimaciones se hospedan en hoteles y hostales

más transitado por los peregrinos que llegaron a santiago de compostela

los datos por sí mismos ponen en evidencia el valor que el camino tiene como elemento de intercambio cultural de fusión de nuestra cultura y paisaje

me voy a centrar en lo que me compete en la variedad cultural en la vertiente cultural del camino de santiago y en su condición de patrimonio cultural es un bien

conjunto monumental así reconocido por un decreto del gobierno vasco el año dos mil y ha tenido diferentes evoluciones en un primer momento se favoreció más

que el propio trazado del camino eso provocó una indefinición sobre su recorrido que se modificó en dos mil doce mediante el decreto dos de ese mismo año por el que se delimitó el trazado del camino que actualmente conocemos

se definió entonces el régimen de protección tanto del camino como de los bienes afectados se mantuvieron para ello

o lugares históricos por los que atravesaba la vía y por otro se puso especial intención en el propósito de unir de manera física los caminos históricos y calzadas públicas evitando siempre que fuera posible

resultó un itinerario que es el que ahora conocemos que es el resultado

destacan los elementos de patrimonio cultural de los lugares que atraviesa pero también se permite ver la evolución cultural social y económica

efectivamente comparto con usted que tenemos un bien importante y que además

con el camino de la costa que atraviesa gipuzkoa y bizkaia y por el camino del interior que recorre gipuzkoa eta araba

está en proceso de modificación ya que se ha visto una necesidad para su

no con el objetivo de modificar ni el trazado ni los elementos de los listados ni el régimen de estos pero sí con el objetivo de aclarar los regímenes de protección en función de su naturaleza urbana o urbanizable en este sentido

se ha publicado en el boletín oficial del país vasco la resolución del viceconsejero de cultura

al trámite de información pública y audiencia estas modificaciones van en línea con las que otras comunidades autónomas están desarrollando

el año dos mil veinte encargamos un trabajo de auditoría técnica del camino y en esa auditoría se identificaron cincuenta y tres incidencias y se ha cometido una intervención sobre las mismas que se ha basado principalmente

reinstalación de hitos de madera y reinstalación de placas y flechas y se han llevado a cabo actuaciones donde ha sido necesario

munitibar arbatzegi gerrikaitz mendata morga zamudio barakaldo abanto zierbena muskiz

asimismo desde la dirección de patrimonio gracias a la relación y la colaboración que mantenemos con las asociaciones de amigos del camino

por ejemplo caídas de árboles o mojones ocultos por la vegetación sobre los que actuamos en colaboración con las asociaciones los ayuntamientos correspondientes o las diputaciones forales como tercera línea quiero destacar también la relación con el tejido asociativo

estas asociaciones desarrollan un trabajo enorme durante largos años sin su trabajo su dedicación y su compromiso no sería posible el mantenimiento de esta vía es justo reconocer por tanto su pasión y su entrega y también destacar que probablemente estas asociaciones como muchos movimientos asociativos en euskadi se encuentran ante el reto del relevo generacional algo que no solo ocurre en euskadi en ese sentido septiembre tendrá lugar en galicia una cumbre a nivel estatal de asociaciones de amigos y amigas del camino que se celebrará en el marco del xacobeo dos mil veintiuno dos mil veintidós

la cuarta línea de trabajo tiene que ver con la puesta en valor y difusión del camino de santiago como patrimonio cultural destacaré tres actuaciones concretas que vamos a impulsar en los próximos meses por un lado las jornadas tituladas el camino de santiago del norte un gran itinerario cultural europeo en la encrucijada de un futuro sostenible

marco de los cursos de verano de la upv este verano por otro lado en dos mil diecinueve firmamos un protocolo de colaboración con la prefectura de mie en japón con el objetivo de trabajar proyectos de colaboración e intercambio cultural y como resultado de ello

del camino de santiago a su paso por euskadi como

también declarado patrimonio de la humanidad en ese marco del protocolo la prefectura

con materiales ofrecidos por nuestro departamento y a la inversa estamos organizando una exposición sobre el camino kumano kodo en euskadi que arrancará en irún en septiembre

en tercer lugar estamos celebrando una serie de materiales de divulgación

se trata de unas postales una por cada elemento cultural del camino en las que se ofrece la imagen del elemento una breve explicación del mismo su contexto en el camino

y un código qr que enlaza con la página web web que precisamente estamos

está actualizada la información relativa al camino de la costa con ciento cuarenta y dos fichas y estamos a punto de publicar la relativa al camino del interior con otros noventa y seis elementos y en tercer lugar estamos elaborando la información de los pequeños caminos alternativos otras treinta fichas y por último quiero destacar nuestra participación en el consejo jacobeo la próxima reunión está prevista para el día cinco de julio

que tiene como finalidad facilitar la comunicación entre la administración general y las comunidades autónomas relacionadas con el camino de santiago estas son

para la protección conservación y puesta en valor del camino de santiago eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna barrio jauna zurea da hitza

gracias presidenta gracias señor consejero efectivamente hay que hacer cosas

este año de parón turístico de parón cultural de

y de volver a aprovechar estos años que van a ser

del camino de santiago para abordar una serie de actuaciones yo creo que

que veremos cómo se materializa con la modificación de la calificación y protección patrimonial yo creo que es algo exigible esa revisión y

esa promoción que va a hacer que luego se desarrolle y que se vayan ampliando los valores culturales artísticos

en todos los sentidos desde luego a la vista de lo que hoy existe las partidas son insuficientes dentro de lo que es el presupuesto en relación con este tema que no sé a qué programas habrá que acudir para poder gastarse más

y a la vista vuelvo a decir de ese plan nacional de xacobeo una mayor implicación yo no vamos a estar solamente pendientes de lo que gaste el gobierno central sino que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo suplementario del gobierno central lo va a hacer en el ámbito patrimonial el ámbito de la recuperación de algunos edificios pero yo creo que es bueno también que el gobierno

cultural de referencia de atracción internacional yo en ese sentido sí que es cierto que a la vista de la presentación el otro

dieciocho del plan turístico del gobierno

a la par si están colaborando si dentro de esos convenios que están previstos que se puedan hacer en relación

de ese dinero hay un acuerdo y yo creo que ese es el ámbito

con el gobierno en este caso que ya tiene un plan un plan concreto un plan

y la colaboración con las comunidades autónomas las comunidades autónomas

en dos mil diez en euskadi en dos mil diez participó muy activamente en ese

en relación con un presupuesto con un presupuesto

que estaba ahí que desde luego se hicieron muchas actividades en aquel sentido en los municipios además

actividades en colaboración con la sociedad estatal de conmemoraciones culturales hubo muchas actividades culturales en aquel dos mil diez que luego se prolongaron en todo el dos mil once en colaboración además algunas de ellas con otras comunidades y elementos de referencia hoy nos ha hablado de alguna cuestión que tiene que ver con otro país con japón pero en aquel momento

interesante de promoción en aquel momento en dos mil once donde después del jacobeo dos mil diez se participó

en la recuperación del legado histórico a través de especialistas en la materia se llevaron a cabo muchas conferencias sobre los caminos y las redes en aquel momento se colaboró con por ejemplo entre otras iniciativas con viajes a través del mar con la escuela

con algunas iniciativas también marítimas del camino en ese sentido

en colaboración con la upv en esta vez se repite y hubo una campaña de cara a la sensibilización se organizaron

jacobea en el país o sea que yo creo que en ese sentido pues hay iniciativa vemos que hay disposición ahora tiene que haber

por aprovechar esta oportunidad porque no es que estemos haciendo algo que pase o que convenga es algo que es aprovechar oportunidades y en este caso oportunidades que nos van a enriquecer cultural

presidenta y buenas tardes a todas y todos zeuk ere